y de coches policiales debidamente identificados contribuye en principio de manera positiva

no es evidentemente el único factor pero si tiene esa vertiente positiva de transmitir seguridad y entendemos que puede contribuir mucho como elemento

ustedes señora consejera han anunciado e informado en reiteradas ocasiones de la adopción de medidas para incrementar esta presencia de agentes de la ertzaintza en nuestras calles

zonas urbanas y rurales anunciaron en julio pasado la incorporación de más agentes a las comisarías la adopción de nuevos métodos de patrullaje

e incluso la modificación de las contravigilancias para los casos de violencia de género y violencia doméstica medidas todas ellas que nos parecen adecuadas

qué han aportado estas medidas qué resultados concretos han tenido estos planes a la hora de mejorar los servicios de seguridad ciudadana que se ofrecen desde las comisarías

una preocupación que parece crecer en la sociedad la preocupación por el incremento de delitos y faltas relacionados con el robo en domicilios caseríos

han detectado ustedes señora consejera este incremento les traslada la ciudadanía esta preocupación

egun on efectivamente el hecho de estar presentes físicamente en el paisaje social de la ciudadanía contribuye a mejorar la sensación de seguridad que la propia ciudadanía percibe y transmite

constituye un termómetro importante a la hora de definir los servicios de seguridad en el tiempo que llevamos de legislatura

y en concreto nos han permitido incorporar más agentes a las comisarías para tareas de seguridad ciudadana

reducción de la necesidad de servicios de protección a las personas amenazadas la unidad de protección y seguridad ha reducido mucho el número de agentes lo que nos ha permitido contar con más ertzainas que entre julio y septiembre se han ido incorporando

lo mismo ha ocurrido con los agentes que conformaban la unidad de acompañamiento al asumir las comisarías

en la atención a las víctimas de violencia doméstica y violencia de género en julio se incorporó también la promoción

de ellos y de ellas fueron a las comisarías a labores de seguridad ciudadana por tanto un total de más de cuatrocientos agentes en seguridad ciudadana en comisarías principalmente en gasteiz donostia

eibar y beasain aquellas que más necesidades de personal presentaban

estas incorporaciones coincidieron también en el tiempo con el impulso

patrullaje que está orientado a la vigilancia a la observación a la investigación pero sobre todo a la prevención la experiencia piloto que se hizo en tres

a partir de las cuales se ha extendido a otras comisarías ha sido positivo

total de prevención se han visto incrementadas en un doce coma cinco por ciento respecto a dos mil doce pero más allá de lo que significan estos datos también me ha trasladado usted una preocupación que parece crecer en la sociedad la preocupación por el incremento de delitos y faltas relacionadas con los robos en domicilios

por desgracia la relación causa efecto entre las medidas adoptadas y los resultados no suele ser correlativo ni inmediato

que hayan podido ejercer sobre los delincuentes que se dedican a apoderarse de lo ajeno bien en concentraciones multitudinarias bien en zonas

las medidas que vamos adoptando requieren de más tiempo para una evaluación más ajustada a la realidad en este sentido la preocupación ciudadana

y hurtos persiste no obstante animamos a la ciudadanía a que siga

y que no por el hecho de que el robo sea frustrado dejen de denunciar pero subrayo que en lo que va de año la tasa de delitos y faltas han mantenido los parámetros equiparables a los países más desarrollados y a las tasas de años anteriores estamos en cuarenta y uno delitos por cada mil habitantes esto por supuesto no impide que sigamos atentos

en este sentido la organización de la nueva estructura reforzará esta política preventiva desde la inteligencia policial la investigación integradas en las políticas de seguridad ciudadana
integrada en esas políticas de las propias eskerrik asko beltrán de heredia anderea

y que no tuvo el respaldo de otros grupos se firmó una enmienda de transacción entre el grupo nacionalistas vascos el grupo popular y upyd

en el que trabajamos y no nos hemos olvidado es un hecho que en los últimos años paulatinamente ha aumentado la demanda quirúrgica debido a nuevas técnicas quirúrgicas y anestésicas la obtención de mejores resultados con la cirugía

y subsecuente incremento de patologías relacionadas es normal

y envejecida como la nuestra y es común al resto de sociedades europeas ante este fenómeno

se traduce en un incremento de sus recursos un incremento también de su productividad la incorporación de mejoras tecnológicas y también la mejora de las instalaciones y no esta legislatura las precedentes han sido en la misma línea

somos más resolutivos también se recurre como es lógico al incremento de recursos propios

y a la concertación externa para dar respuesta a esta demanda aun así el objetivo de este departamento es

la concertación externa como reflejan los datos de este año dos mil trece y como también han reflejado

que usted conoce en el año dos mil trece no ha aumentado la autoconcertación ni la concertación externa respecto al ejercicio anterior y sí la actividad quirúrgica realizada con recursos propios bi mila hamairuko

quirúrgicas están en parámetros aceptables y llevamos un seguimiento frecuente

el estudio que usted reclama se está haciendo y se verá en la comisión de salud de este parlamento eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna ubera

resultados señora ubera resultados nosotros se los enseñaremos a final de año o

desde su grupo nos han repetido en varias ocasiones especialmente en las instituciones en las que ustedes no gobiernan que el estado de los servicios es que hagamos todo con recursos propios

en el departamento de salud tan solo el siete por ciento del presupuesto

es decreciente y es de las partidas más pequeñas de personal nosotros estamos convencidos de que la filosofía de un único proveedor no es la más adecuada le pondré un ejemplo el oncológico dispone de tres quirófanos están concertados los tres

en cuanto a la autoconcertación si se eliminase al cien por ciento para suplirla por nuevos turnos de tarde tendríamos serias dificultades para encontrar personal

allí después de la baja maternal y que no había para contratar hay ámbitos donde el mercado es escaso y no todos los profesionales quieren aceptar

ni todos los profesionales son capaces de hacer determinadas técnicas no es fácil nuestro objetivo principal lo conoce usted bien es dar un buen servicio a las personas como parte de este servicio nos proponemos

prestada por el personal más entrenado y cualificado y coincido plenamente con usted y lo sabe

universal y de calidad eskerrik asko eskerrik asko

señor lehendakari usted y el consejero de salud y consumo nos han pedido prudencia en todas las ocasiones en las que este grupo se ha interesado por las actuaciones de su gobierno

mi grupo ha actuado con la responsabilidad que le compete a quienes estamos desde la oposición ejerciendo el control sobre lo que haceo no hace el gobierno desde el mes de febrero en el que se debatió este asunto por primera vez no hemos encontrado más que un frontón donde rebotan nuestras preguntas y nuestras iniciativas iniciativas que siempre han respondido a las preocupaciones que nos trasladan las personas afectadas esas personas con las que su gobierno insiste estar muy comprometida

se encuentran en un proceso difícil estando en manos del juez competente la resolución del concurso de acreedores y seguimos sin saber en el ámbito de los consumidores y usuarios qué esperanzas ofrecen ustedes a quienes tienen atrapados sus ahorros en esas aportaciones

últimos en la fila para recuperar lo invertido por delante de los socios cooperativistas

por aportaciones financieras subordinadas de eroski están asistiendo con preocupación a la bajada de la cotización de las mismas en el mercado secundario

ha habido algunas informaciones periodísticas no desmentidas por su gobierno sobre gestiones que se estarían haciendo con entidades comercializadoras

por eso esta cámara desde la prudencia pero también desde la responsabilidad de atender lo que las personas afectadas nos trasladan y nos solicitan debe saber

y cauces de solución por eso señor lehendakari le pregunto cuál es la propuesta que el gobierno vasco a través de kontsumobide ha trasladado para dar una solución a las personas afectadas

sarasua andrea egun on berriro en primer lugar y como bien sabe usted señora sarasua y el resto de miembros de esta cámara

se está trabajando con toda la intensidad de la que somos capaces para intentar dar una solución a las aportaciones financieras subordinadas el pasado veintitrés de septiembre la directora de kontsumobide comparecía en comisión parlamentaria

y el trabajo que se está desarrollando expuso cómo las dos entidades emisoras trasladaron en el mes de agosto su deseo expreso de abordar las situaciones de modo independiente y en este sentido se está trabajando en lo que se refiere a las aportaciones financieras subordinadas de eroski a iniciativa de kontsumobide se están manteniendo reuniones y contactos frecuentes entre la entidad emisora

y las personas afectadas fundamentalmente a través de las federaciones de personas consumidoras el proceso no ha finalizado

sigue abierta en lo que se refiere a las aportaciones financieras subordinadas de fagor el hecho de que fagor se encuentre actualmente

en concurso de acreedores supone que la mediación carezca a día de hoy de una de sus partes implicadas pero el trabajo de mediación continúa realizándose

señor consejero cada viernes ustedes transmiten incomodidad con lo que se les pregunta la pasada semana lo explicitó ante una pregunta de mi compañero el señor vicente reyes y desde el máximo respeto que tengo al lehendakari a su gobierno pero también desde el máximo respeto que tengo a toda y cada una de las personas afectadas

que es para lo que estamos aquí y que la forma de hacerlo lo decidiremos el grupo socialista nosotros no decidimos no dar respuesta a una inquietud ni decidimos que la anterior directora de kontsumobide decidiera escudarse

para eludir ofrecer soluciones creemos que se ha tardado mucho en actuar y creemos que esa tardanza ha respondido a una actitud manifiesta de esta cámara

para derivarlas a solo algunas de las entidades financieras comercializadoras no hemos buscado en ningún momento causar problemas añadidos a los que

estábamos buscando y estamos buscando soluciones concretas para los cuarenta mil afectados que desde el desconocimiento no pueden disponer de sus ahorros para atender sus necesidades porque están en un producto cuya liquidez es hoy más discutible que nunca por eso queremos saber si se les va a ofrecer un cauce de esperanza a las diez mil personas que tienen sus ahorros en fagor y a las otras

y de paso ya que en octubre desestimaron nuestra propuesta para eliminar esa figura engañosa para los ciudadanos nos gustaría que nos adelantasen

es lo que desde la oposición del grupo parlamentario nos corresponde hacer y es lo que le planteamos eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

señora sarasua le respeto su preocupación estoy seguro que sincera

que todos los grupos que estamos representados en esta cámara la compartimos el tema de las aportaciones

pero tenemos que ser conscientes de la delicada situación así como del trabajo que está suponiendo la labor de mediación usted misma en este micrófono dijo hace unas semanas que hablaba con la directora de kontsumobide y que probablemente conocía más de lo que es prudente decir en público

nosotros vamos a seguir trabajando desde la discreción y la responsabilidad estoy seguro

continúen respetándola como lo han hecho y aprovecho para agradecerles su actitud

a fecha veintidós de noviembre el gobierno a través de kontsumobide no hemos trasladado todavía propuesta alguna puesto que kontsumobide mantiene abierta la mediación con las entidades y comercializadoras para posibilitar la presentación de la propuesta pero esté segura que estamos trabajando con mucha mucha intensidad

es pues porque o no es fácil el tema que no lo es o porque no hemos sido capaces hasta la fecha eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

zurea da hitza gracias señora presidenta lehendakari hace unas horas podíamos leer y escuchar sus palabras en las que
decía que garantizaba que el próximo año empezaremos a levantarnos

nuestra pregunta es valora el lehendakari que el gobierno vasco está siendo eficaz en la gestión de medidas de estímulo y confianza para la economía vasca o dicho de otra manera en qué a contribuido usted y su gobierno para que ese futurible

en un día que exige un compromiso en este caso continuado

son iniciativas propias adoptadas a raíz de la permanente interlocución con los agentes económicos y sociales por ejemplo rigor y consolidación fiscal

doce de septiembre con el gobierno español la sociedad sabe que este gobierno ni va a gastar ni gasta más de lo que tiene

reforma fiscal consensuada entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi también

otro acuerdo con las tres diputaciones forales partido nacionalista vasco partido popular bildu para invertir ciento ochenta millónes en proyectos de estímulo a la economía otro plan de empleo con sesenta y cinco iniciativas y el compromiso de consolidar cuarenta y dos mil empleos presentado en marzo

en el próximo mes de diciembre otro acuerdo para poner en marcha treinta y siete planes comarcales de empleo con veinte millónes de euros

otro reducción de la estructura institucional en un veinte por ciento otro fondo de financiación de circulante para las pymes y autónomos acordado con las instituciones financieras entidades financieras diez y dos sociedades de garantía recíprocas otro avales extraordinarios de cien millónes de euros

para proyectos industriales y catorce millónes de avales para el sector naval otro programa de apoyo financiero a la exportación junto con las cámaras de comercio

tras el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

la estabilidad presupuestaria y la estrategia económica favorecen la confianza en la inversión y el consumo me pregunta si estas medidas están resultando eficaces mi respuesta es sí

que las correspondientes al presente ejercicio y no son previsiones económicas solo de este gobierno la economía vasca va a salir de la recesión va a mejorar

sino que trabajaré para que todo lo que estoy diciendo esté basado en hechos concretos ez dago dudarik quiroga andrea ekonomia berpizten ari dela

lehendakari cuando le pedíamos que nos dijera cómo había contribuido este gobierno no lo digo con futuribles lo digo con hechos

de todas esas medidas no son realidades no son realidades que se estén aplicando y usted lo sabe

todo eso no se ha puesto en marcha y usted lo sabe por eso lo que le pregunto es dígame

sola medida real una medida que tenga una eficacia real en el año dos mil catorce porque sea arriesgada estructural de fondo

que en euskadi el año que viene vamos a estar mejor dígame algo de valor añadido en su gestión para garantizar la recuperación económica

de la inercia del mercado europeo y español cuya solvencia hoy sí tiene que ver con el esfuerzo de todos los ciudadanos la determinación de un gobierno que sí tiene un objetivo

en el exterior y seguridad en nuestras opciones de futuro dígame qué modelo de país y de futuro tiene su gobierno el pnv para euskadi diga a los ciudadanos cómo vamos a afrontar los vascos los retos de un nuevo mercado global hoy la realidad

este país ofrece pocos síntomas para sacar pecho lo que ha quedado claro y en evidencia durante todo este año de su gobierno es que el pnv ya no marca ninguna diferencia en gestión su gobierno se diluye porque en lo que va de año

en un tres coma siete por ciento en lo que va de año y sin contar aún fagor y sus consecuencias

empresas en euskadi seguimos destruyendo empleo los costes laborales siguen mermando nuestra competitividad y lo que nos parece más alarmante lehendakari

es que no hay una apuesta clara decidida políticamente ejemplar para reconocer la figura y la labor empresarial

se desprecia políticamente a quien genera empleo se castiga el fracaso y se sospecha del éxito se exige inversión crecimiento y empleo

que lo procura se avalan campañas para incluso deslegitimar al empresario mientras su gobierno tolera que se ponga en solfa al empresariado vasco

necesitamos financiación necesitamos arrojo político y determinación para reactivar nuestra economía a usted le eligieron los vascos para sacar a euskadi de la crisis

por no enfrentarse a esa dura realidad por no tener valor

en euskadi cada vez es más creciente la percepción lehendakari de que nos están metiendo de lleno en el agujero de la crisis económica

me preguntaba usted por la valoración si está siendo eficaz en la gestión de medidas de estímulo y confianza para la economía vasca le he citado once medidas que hemos aprobado once de las cuales algunas las hemos aprobado con el partido popular

no sé de dónde sale entonces la apelación a si futuribles o no si las hemos aprobado incluso con usted en todo caso quiero recordarle que hemos recibido una euskadi en recesión

el consumo final en negativo la demanda interna en negativo algo de esto sabe usted no señora quiroga

también las exportaciones van a crecer ayudamos a generar confianza los indicadores negativos serán positivos el próximo año es por lo que me ha preguntado usted señora quiroga

no caminamos solos mantenemos una relación con todo tipo de agentes económicos
incluso con los empresarios más allá de lo que usted cree eskerrik asko lehendakari jauna

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari han sido

en el último mes en concreto desde que el pasado día veintiuno de octubre el tribunal europeo de derechos humanos dictase la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina parot para el caso de inés del río cuarenta y uno

presos con condenas de decenas y centenares de años de cárcel han salido ya de las cárceles y podrían llegar a salir muchos más

y responsables de crímenes repugnantes es poco probable

vayan a ser homenajeados o recibidos entre vítores y aplausos pero sí es seguro que una parte de la sociedad vasca

pretenda y de hecho históricamente así ha sido pretenda homenajear públicamente y enaltecer y recibir con honores a presos de eta excarcelados actitud que vulnera la legalidad vigente y la dignidad

de la propia sociedad democrática actitud por lo tanto que supone un insulto

y en general para la propia sociedad vasca señor lehendakari

no le pregunto por la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina parot no le pregunto esto le pregunto qué es lo que va a hacer el gobierno vasco

impedir homenajes a etarras excarcelados y qué es lo que va a hacer el gobierno para defender la dignidad de la sociedad democrática

de las víctimas del terrorismo qué ha hecho y qué es lo que va a hacer gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro le voy a responder de forma muy clara el departamento de seguridad del gobierno vasco

como consecuencia de la vulneración de la legalidad vigente a la que usted se refiere en la justificación de su pregunta si se comete cualquier hecho delictivo en la comunidad autónoma

en el momento en que se produzca señor maneiro pondrá el tema en conocimiento de la administración de justicia eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias lehendakari en nuestra opinión eso no es suficiente hay que hacer más

contundente por parte del gobierno vasco hace falta un discurso claro y contundente por parte del lehendakari porque la realidad a día de hoy es que las víctimas del terrorismo se sienten solas se sienten abandonadas se sienten preocupadas y están sufriendo por la situación actual excarcelamiento de presos etarras y de determinados homenajes que ya se han producido en los últimos días por lo tanto yo creo que este gobierno debe hacer básicamente tres cosas debe mostrar

su cercanía y su solidaridad expresa con las víctimas del terrorismo debe arropar

del terrorismo y hacer que se cumpla la ley tanto la ley de víctimas nacional como la ley de víctimas de euskadi para impedir que sean

públicamente y debe hacer alguna cosa más creo que deberíamos los demócratas instar a la fiscalía general del estado a mantenerse vigilante

que hayan llevado a cabo o realicen actos públicos que entrañen descrédito menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo incluso

que en los últimos días han lanzado discursos de legitimación y defensa del terrorismo creo que eso también deberíamos hacer la ertzaintza también debe mantenerse vigilante para evitar para la realización de actos públicos alguno ya se ha producido que entrañen descrédito para las víctimas del terrorismo todo esto es lo que le pedimos y un discurso contundente

en defensa de la democracia y en defensa de la sociedad vasca democrática y en defensa de las víctimas del terrorismo eso es lo que nosotros le pedimos eskerrik asko

que ya planteó cuestiones como estas que usted ha planteado la semana pasada y que tuvimos ocasión de responder

en todo caso no es suficiente es necesario un discurso claro es un discurso contundente es una necesidad de cercanía con las víctimas

no es consciente tampoco de lo que este gobierno hace en relación a la proximidad con las víctimas con los actos que esta misma semana hemos celebrado no ya el domingo pasado sino esta misma semana hemos celebrado en jornadas para con las víctimas del terrorismo pues vamos a seguir insistiendo en este tipo de plenos con preguntas al gobierno sobre lo que ya está haciendo el gobierno y que usted le exige que haga

y perseguirá todas las actuaciones calificadas como delitos usted se empeña en ponerse la venda antes de la herida señor maneiro usted se empeña en emplazar permanentemente a la sociedad vasca para usted la sociedad vasca en su conjunto

para usted la sociedad vasca en su conjunto es sospechosa no una parte sino la sociedad vasca

y le exige un plus de beligerancia un plus de defensa de los derechos humanos un plus de defensa de la democracia usted a la sociedad vasca en general se lo exige la sociedad vasca ha dado muestras de actitud a favor de la paz

de actitud a favor de los derechos humanos y de la democracia

muy por encima de la que demuestran determinados responsables políticos señor maneiro empeñados en utilizar la violencia y el terrorismo como

que no ha habido homenajes que hayan supuesto un delito señor maneiro sabe que no ha habido homenajes que hayan supuesto un delito

no ha habido homenajes y punto no voy a dedicar tiempo y esfuerzo en relación a algo que no existe eskerrik asko eskerrik asko

voy a ser breve en esta interpelación porque quiero

qué es lo que me va a responder cuáles son las explicaciones que me va a dar para explicar la presencia de víctimas de abusos policiales en las aulas quiero escucharle atentamente

el responsable de paz y convivencia y la consejera de educación política lingüística y cultura presentaron las líneas del plan de paz y convivencia en el ámbito

de víctimas del terrorismo en las aulas y donde ahora se pretende introducir también testimonios de personas que sufrieron abusos policiales

a tres personas que sufrieron abusos policiales para que ofrezcan

a los alumnos de los centros vascos que lo soliciten las asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo ya han criticado esta medida por distintas razones nosotros le interpelamos

los propósitos últimos los propósitos verdaderos los propósitos reales que se buscan con la participación de personas que sufrieron abusos policiales en el programa de paz en el ámbito educativo

qué se busca realmente qué se pretende cuál es el objetivo real la presencia de víctimas del terrorismo en las aulas

no pretende digamos hacerles un favor a ellas sino sobre todo lo que se pretende con esa presencia de las víctimas del terrorismo es deslegitimar el terrorismo desde las aulas por qué por un hecho fundamental porque hay una parte de la sociedad vasca

reducida de la sociedad vasca pero una parte de la sociedad vasca que sigue justificando el terrorismo por eso nosotros consideramos que es tan importante la presencia de las víctimas

sin embargo no hay ningún grupo político no hay ninguna organización

los abusos policiales esa es la diferencia sí hay grupos políticos incluso alguno presente en esta cámara que justifica el terrorismo de eta

abusos policiales esa es una diferencia absolutamente fundamental que creo que justifica perfectamente la necesidad de que las víctimas del terrorismo den testimonio en las aulas y expliquen qué es lo que ha ocurrido en euskadi en las últimas décadas

le ha pasado señor lehendakari al partido nacionalista vasco en los últimos años que ha pasado de considerar abrupta la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas

y por tanto desaconsejable esto lo ha defendido el partido nacionalista vasco desaconsejable

de víctimas del terrorismo en las aulas a una vez que ya se ha consolidado o se ha llevado a cabo esa presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas pasar a considerar en pocos años

indispensable la presencia en las aulas de las víctimas policiales por qué

las razones que explican la presencia de las víctimas policiales

lo abrupto o no estará en función del método seguido o

en su caso en un inicio pero no por lo que sea la participación de las víctimas en las aulas no me queda claro en ningún caso si quiere que este gobierno plantee la presencia de las víctimas o no en todo caso señor maneiro el pasado once de noviembre y haciendo relación

la consejera de educación política lingüística y cultura junto con el secretario general de paz y convivencia entregaron a todos los grupos parlamentarios el documento titulado bases y proyectos del plan de paz y convivencia en el ámbito educativo ese mismo día se reunieron también con la totalidad de los agentes educativos para presentarles

el día once de noviembre se abrió un plazo de tres semanas para recibir aportaciones al mismo el gobierno está trabajando este tema con una dinámica de trabajo abierta y transparente

hemos expuesto con transparencia y claridad las razones que usted

los objetivos los medios y los calendarios de trabajo hemos abierto la puerta de la escucha el diálogo y el consenso a los grupos parlamentarios como el suyo así como a los agentes educativos y sociales nos encontramos por lo tanto en la fase de escucha y de diálogo

orain adi adian programa ekimen guzti horren jarraipena da sí señor maneiro el módulo educativo adi adian no es nuevo

es fruto de un largo trabajo realizado por las instituciones vascas y conozco personalmente bien sus antecedentes

a raíz de los trabajos de la comisión de derechos humanos lo conozco personalmente esta resolución dio origen a la primera ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo aprobada el diecinueve de junio del dos mil ocho

ese mismo año dos mil ocho se pusieron en marcha los primeros programas didácticos en las aulas su continuidad han sido los denominados programa de víctimas en las aulas o programa de víctimas educadoras el programa adi adian por lo tanto da continuidad a todas estas iniciativas a un permanente compromiso institucional

actualiza y trata de mejorar aquellos aspectos que se encontraban menos desarrollados como su implantación o su comunicación a los agentes educativos

que contando con el perfil educativo requerido y participando en la necesaria formación previa tengan reconocimiento institucional dentro de nuestro marco normativo le quiero recordar que tanto las víctimas del terrorismo de eta como las víctimas de abusos policiales cuentan con ese reconocimiento institucional señor maneiro

que el gobierno vasco está cumpliendo al pie de la letra con lo que establece el decreto del currículo de educación básica

le voy a leer de forma literal lo que dice este decreto vigente desde hace más de tres años

el necesario rigor conceptual que debe tener el acercamiento didáctico a los derechos humanos es perfectamente compatible con la búsqueda de empatía con las víctimas de su computación mediante el conocimiento de su testimonio

este módulo educativo cumple también al pie de la letra con las conclusiones y recomendaciones que en la anterior legislatura

el consejo escolar recomendó y subrayó en aquel momento que la centralidad de esta iniciativa debe situarse en el proceso educativo y en su protagonista principal

señor maneiro en todo lo que hacemos pero especialmente en esta materia tenemos un compromiso muy serio con el rigor no estamos para frivolidades ni para demagogias este módulo educativo se puede entender adecuadamente con una única condición leerlo desde el rigor la buena voluntad

el gobierno ha realizado una propuesta abierta que desarrolla un módulo educativo lo hemos presentado y estamos dispuestos a integrar las aportaciones recibidas

las directrices europeas y las recomendaciones del consejo escolar de euskadi lo presentamos a los grupos parlamentarios para su contraste y sobre todo lo vamos a acordar con la comunidad educativa la destinataria y protagonista a la hora de dar continuidad a este módulo resumo

módulo este programa está abierto a todas las aportaciones lo enriquecedor sería aportar y ayudar pero confirmo una vez más que el único interés es

el eje y la clave de este módulo son el alumno y alumna comprenderlo y gestionarlo desde la óptica mencionada es clave ninguna violencia ninguna señor maneiro ninguna violencia ha tenido nunca razón de existir

han padecido sin causa todas estas víctimas tienen el mismo derecho a aportar su testimonio para denunciar una injusticia que jamás se debería haber producido

y yo le contesto el interés de este programa es pedagógico es poner de manifiesto la injusticia de la violencia por eso las víctimas que participan

determinada y reciben en su caso una invitación de los propios centros para participar en este módulo educativo así lo vamos a hacer señor maneiro

uno de los ejes centrales pero es uno el eje central de este gobierno y así lo vamos a mantener con el espíritu abierto y con la determinación de avanzar

gracias lehendakari cuando se planteó la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas hubo un partido político que lo criticó

y fue el partido nacionalista vasco esto es una realidad puso pegas

esta es la realidad y en todo caso los gobiernos nacionalistas anteriores nunca plantearon cosa parecida

de que las víctimas del terrorismo tuvieran presencia en las aulas por eso ahora me sorprende que el gobierno del partido nacionalista vasco quiera que tengan también presencia las víctimas de abusos policiales en todo caso

si finalmente se lleva a cabo esto nosotros pensamos que sería absolutamente inaceptable que pudieran ser los colegios los que decidieran qué damnificados

en ningún caso debe provocar una equiparación entre víctimas y creo que se lo han dicho incluso también otros representantes políticos del arco parlamentario

asociaciones y es fundamental también que no se llegue a entender o no se traslade la idea de que existió

abusos policiales es decir que nuestros jóvenes no llegaran en absoluto a esa conclusión de que quizás existió eta por determinadas causas y esto a nosotros nos parece absolutamente fundamental

yo le pido que esto lo cumpla el gobierno y esté ante estas condiciones en todo caso creo que a ustedes no les importan las víctimas de abusos policiales y no me creo que ustedes busquen los objetivos que dicen el interés pedagógico creo que ustedes buscan quitar valor al discurso de los agredidos por eta creo que ustedes buscan diluir el terrorismo

de maldades creo que ustedes buscan vendernos la teoría del conflicto político otra vez creo que ustedes buscan blanquear

y creo que buscan blanquear el daño provocado por eta y desviar la atención o por decirlo de una forma en que

todas las víctimas para que no haya ninguna creo que ese es el propósito del gobierno vasco y ya que me lo pregunta

era el grupo de la oposición ya que me lo pregunta nosotros nos oponemos a la presencia de las víctimas policiales en las aulas por todas estas razones

con todo el respeto a las víctimas policiales con todo el respeto que merecen creo que su presencia podría provocar todo esto

el gobierno vasco y algo fundamental

la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas es fundamental en euskadi porque es en euskadi donde hay una parte reducida pero hay una parte de la sociedad vasca que sigue justificando el terrorismo

mientras que no hay ningún grupo político no hay ninguna organización no hay ningún representante político conocido que justifique la violencia policial habida en el pasado nadie

que debe asegurarse la presencia de las víctimas del terrorismo y no la presencia de las víctimas policiales con todo el respeto a las víctimas policiales

por estas razones que yo le he explicado gracias eskerrik asko maneiro jauna lehendakaria zurea da hitza

señor maneiro cuando yo le he pedido honestidad pensaba que

a cumplir en la segunda intervención y le vuelvo a pedir honestidad mire antes de que usted fuera parlamentario el que le habla también era parlamentario

las resoluciones que este pleno en legislaturas anteriores aprobó teniendo en consideración

y este parlamentario también participó en lo que fue en la elaboración

aprobada después de que yo dejara de ser parlamentario y cuando hace referencia a lo que es la apelación al partido nacionalista vasco mire puede preguntar en el gobierno anterior en el gobierno anterior lo que desde la dirección de víctimas del terrorismo ha sido el compromiso del partido nacionalista vasco que presidía yo mismo

personal para hablar de esta cuestión en relación a lo que es la honestidad con la que usted se debería producir ante el partido nacionalista vasco puede preguntar al gobierno anterior

lo que ha sido la colaboración del partido nacionalista vasco en esta cuestión y en todas las que han sido referidas a las víctimas del terrorismo no voy a entrar en los tópicos de que no me va a dar usted lecciones de nada no me gustan esos tópicos en todo caso me preocupa

siempre en este tema cargadas de un juicio de intenciones un juicio de intenciones que se convierte además en una acusación absolutamente injusta

yo personalmente y el partido nacionalista vasco tenemos la conciencia tranquila tranquila también en la autocrítica que hemos hecho del pasado en la relación

que hayamos ofrecido a las víctimas del terrorismo y el trabajo que hemos hecho por las víctimas del terrorismo y para muestra está toda la actuación que en legislaturas pasadas

con toda su representación institucional con las víctimas del terrorismo y lo dejo aquí ya orain maneiro jauna berriz ere

en una pedagogía del compromiso señor maneiro un programa que se orienta de modo constructivo a un marco de referencia ético para la convivencia y la prevención de la violencia

la presencia de las víctimas que participan en este modulo solo persigue un objetivo y es promover una experiencia de aprendizaje ético

mediante la experiencia de escucha del testimonio de víctimas

dice que no comparte la presencia de las víctimas de abusos policiales sin embargo al segundo siguiente dice que respeta yo le pido que respete las leyes que respete al consejo escolar que respete lo que es la decisión de la comunidad educativa podría seguir pero creo que es suficiente esto es lo que he dicho lo que dice

que vamos a poner en marcha y no tengan ninguna duda señor maneiro los centros

en uso de su autonomía van a poder elegir si quieren desarrollar este módulo

audiovisual mediante el teatro o de forma directa y presencial el número de víctimas participantes en este módulo es reducido

y para participar en el programa se debe cumplir con un perfil que tiene en cuenta los valores educativos que se persiguen además quienes participen van a recibir una formación específica los participantes deben cumplir con ese perfil y sus características no deben generar interferencias con la labor educativa

provocó una gran catástrofe natural en filipinas y otros países asiáticos que ha causado hasta el momento

y que ha afectado a alrededor de doce millónes de personas entre desplazados personas que han perdido sus hogares etcétera el grupo socialista intentó

se solidarizara con las víctimas que se hiciera eco de las dificultades que se estaban manifestando

y de los problemas de supervivencia que se estaban dando en la zona sobre todo

a intervenir de manera urgente en ayuda de las personas que estaban sufriendo la devastación provocada por la catástrofe natural queríamos simplemente que su gobierno

con ocasión del terremoto que afectó haití en dos mil diez o con la situación de hambruna

en dos mil once la declaración institucional que pretendíamos no fue posible de llevarla a cabo

el ejecutivo no podía comprometer a su gobierno a que los fondos que pudieran destinarse a la ayuda humanitaria correspondieran al ejercicio dos mil trece el grupo socialista como el resto de grupos a excepción del pnv consideramos que

para el ejercicio dos mil catorce como pretendía el grupo que apoya su gobierno asistimos en ese momento a un hecho inédito en euskadi

no tenía instrumentos para articular la ayuda humanitaria a una población que sufría la devastación no se ha decidido nada y tampoco se han hecho previsiones dijo el consejero y portavoz de su gobierno señor erkoreka después de la reunión de su ejecutivo durante muchos años el pueblo vasco y sus instituciones han sido referentes

solidaridad con los pueblos que más necesidades tienen el incremento paulatino de las ayudas

han hecho de este país un ejemplo el rigor y la calidad de ejecución de los proyectos de cooperación han prestigiado a nuestras instituciones y a las organizaciones no gubernamentales

ustedes en este ejercicio dos mil trece han roto con esa trayectoria desde nuestro punto de vista la imposibilidad de que este parlamento se pronunciara e instara actuar en socorro de los afectados por el tifón se debe a dos errores cometidos por su gobierno señor lehendakari uno

y no voy a insistir en ello porque ya hemos debatido suficiente en esta cámara al respecto el otro error puede considerarse más técnico pero en realidad a una absoluta falta de criterio sobre la concepción y el alcance de la idea de solidaridad con quienes sufren necesidad estructural o necesidad coyuntural como son los afectados

ustedes no habían previsto siquiera activar el decreto treinta y uno barra dos mil ocho de diecinueve de febrero

de atender a una emergencia humanitaria no tenían preparado el instrumento que regula las ayudas a acciones humanitarias que efectivamente no se puede saber de antemano cuándo se va a necesitar pero que cuando surge la reacción ha de ser inmediata lehendakari nos preocupa realmente

pero sinceramente nos empieza a preocupar más la concepción que ustedes tienen de la cooperación creemos que no están favoreciendo en sus convocatorias el trabajo sobre el terreno hablan de incrementar en número de becas pero no se refuerza la acción directa

el olvido entre comillas de no tener preparado el dispositivo que pudiera reaccionar

es a nuestro entender un claro ejemplo de abandono por ello nuestra interpelación va dirigida a solicitarle los criterios que en el futuro van a adoptar

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor unzalu vamos a ver si nos entendemos y además

también el gobierno vasco comparte con la agencia vasca de cooperación al desarrollo

el gobierno ya ha anunciado que a través de un procedimiento de tramitación anticipada de gasto

el gobierno a raíz de la situación excepcional acontecida

ha tomado la decisión de adelantar los trámites de forma que estas ayudas públicas destinadas a acciones humanitarias puedan ser recibidas lo antes posible por las asociaciones y organizaciones que llevan años trabajando en la zona hemos tomado

con estas asociaciones y organizaciones que como digo tienen gran experiencia de trabajo humanitario sí le puedo añadir que personalmente

al embajador de filipinas para mostrarle en primer lugar nuestra condolencia

en función de la necesidad detectada por el gobierno de filipinas y la coordinación necesaria al margen de la gravedad del caso concreto que nos ocupa este hecho creo que nos puede servir como oportunidad para transmitir algunas reflexiones sobre los principios y los objetivos que la cooperación vasca para el desarrollo maneja y persigue en relación con esta forma de solidaridad la reflexión compartida por la agencia vasca de cooperación al desarrollo hace referencia a la realidad de las crisis humanitarias toma en consideración por una parte los mecanismos para su atención urgente y a su vez

tendentes a evitar estas crisis o como creo que más nos pueda corresponder minimizar sus consecuencias la estrategia más claramente defendida se decanta por las respuestas estructurales

a dirigir la inversión y el apoyo a actuaciones que ayuden a evitar estas situaciones la realidad que plasma esta reflexión es compartida por los responsables

es también el criterio que aplica el gobierno vasco a través de la agencia de cooperación al desarrollo

la oficina de coordinación de naciones unidas para socorro en caso de desastre con sede en ginebra que estamos siguiendo también

se ha reunido con las diez organizaciones que trabajan en la zona le puedo asegurar que todas ellas

comparten el criterio de orientar la ayuda a la cooperación con una visión de medio

tratando de evitar acciones cortoplacistas o tratando de evitar intervenciones institucionales a golpe de o por

nik konpromiso pertsonala ere badut sin perjuicio por lo tanto señor unzalu de la importancia y la necesidad de las ayudas de emergencia

lo verdaderamente relevante es la acción de ayuda estructural los desastres y las crisis humanitarias pasan a un segundo plano en un periodo de tiempo relativamente escaso no así sus consecuencias que se prolongan en el tiempo en realidad hoy hay un gran número de crisis humanitarias absolutamente

incluso las que usted ha hecho referencia la ayuda de emergencia tiene algo o mucho de coyuntural esto no quiere decir que no sea necesaria pero sí que es preciso ubicarla en un ámbito más general de colaboración

la cooperación para el desarrollo es una acción que tiene que estar presidida por el principio de complementariedad a nuestro juicio

así como también las organizaciones que están trabajando por paliar los efectos de este tifón sobre el terreno esto significa defender que cada entidad debe abordar aquello para lo que esté especialmente capacitada utilizando los recursos existentes de la manera más adecuada para cubrir la finalidad que se persiga beraz

insisto el gobierno convocará de manera anticipada el procedimiento de ayudas

de esta forma posibilitamos la respuesta a la crisis planteada y a su vez lo hacemos a través de la red de cooperación yaexistente comprometida con los

y conocedora de las necesidades sobre el terreno eskerrik asko

bien señor lehendakari agradezco su respuesta pero tengo que decirle

que me parece que no ha entrado usted al fondo de la cuestión que yo le he planteado vamos a ver en este ejercicio dos mil trece

hemos comentado bastante en esta cámara quería

la visión de la cooperación con

pero también la cooperación tiene esa parte coyuntural de respuesta de emergencia ante situaciones como la que estamos aquí comentando

es que ustedes no tenían preparado el dispositivo necesario para actuar inmediatamente pero es que es más tampoco quisieron hacerlo porque ese dispositivo

ustedes tienen un decreto y preparar una orden o una resolución que inmediatamente para este ejercicio

ejecutado en este mismo ejercicio hubiera sido relativamente

con toda la documentación que ustedes tienen en sus archivos es rápido pasar por consejo de gobierno

reservar en el boletín oficial del país vasco un espacio para que esto se publique es relativamente sencillo pero esto no se ha hecho y efectivamente usted dice lo dejamos para dos mil catorce pero qué es lo que ocurre qué es lo que yo le planteaba antes que desde el principio

estas cuestiones coyunturales se pueden dar mire usted señor lehendakari yo el once de marzo de este año

respuesta escrita en ella en esa pregunta primero le decía cuántas convocatorias

y eran nueve convocatorias entre ellas dos para ayudas de acción humanitaria la estrategia marco y la financiación permanente dos había varias sobre el focaz becas organismos

ayudas por equidad de género decreto ciento noventa y siete barra dos mil ocho y el premio ignacio ellacuría nueve convocatorias en dos mil doce y usted me responde

diciendo que en este ejercicio van a convocar como así ha hecho

y becas de especialización en el área de cooperación al desarrollo es decir ustedes no contemplaban en la acción de la agencia vasca que pudiera haber

que exigieran una respuesta inmediata y por lo tanto llegamos a noviembre

con una postura con una acción derivada a dos mil catorce bien alguien

insisto no tenían planteado no tenían esa visión que desde mi punto de vista

es troncal de que tiene que haber también para coyunturas capacidad de respuesta

que ustedes en este ejercicio no tienen propósito de la enmienda porque nos han presentado un presupuesto con dos partidas básicamente en el capítulo cuarto una y en el capítulo séptimo otra que no explicitan absolutamente nada

una partida transferencia para gastos corrientes agencia vasca de cooperación para el desarrollo en el capítulo cuarto de nueve millónes ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve euros

con la misma acepción y que son veinticinco millónes ciento setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno en el presupuesto dos mil doce efectivamente

excesiva parcialización de las propuestas pero es que hay una

minuciosa referencia de todas las convocatorias que iba a haber de todos los objetivos que tenía la agencia y cómo se iba a responder eso es lo que le estoy diciendo si ustedes

tienen previsto ya cuántas convocatorias cómo van a ser dirigidas es decir si ustedes ya contemplan todas las cuestiones que se pueden plantear a lo largo de un ejercicio en cuestión de cooperación por supuesto insisto y comparto con usted

actuación sobre el terreno también pero también las coyunturas hay que hacerlas

preparados para actuar para actuar inmediatamente cuando esto ocurre muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko lehendakariaren txanda

señor unzalu tomo en consideración lo que es su concepción con respecto a la actuación institucional en necesidad de abordar ayudas coyunturales pero permítame que también tengamos otra concepción diferente incluso sobre las ayudas coyunturales de cómo hacerlo de manera coordinada con los centros coordinadores de cómo hacerlo

o de cómo hacerlo incluso en coordinación con las asociaciones que operan sobre el terreno permítame que tenga este gobierno también su propia concepción sobre incluso las ayudas de emergencia

en el último momento era cuáles son los propósitos del gobierno vasco en relación a los criterios que tendrá en cuenta en lo sucesivo respecto a las ayudas a acciones humanitarias se lo he respondido en mi primera intervención no quiero entrar en el debate sobre lo que es el presupuesto de este año dos mil trece y cómo está configurado este presupuesto del año dos mil trece que es un presupuesto prologado del año dos mil doce

no en relación a lo que son los recursos económicos sino a las consideraciones que pueda tener este gobierno para abordar lo que puedan ser las ayudas de emergencia en este contingente señor unzalu este gobierno no ha ocultado en ningún momento la realidad económica y presupuestaria que hemos padecido en el año dos mil trece

hemos presentado la realidad con transparencia lo hemos hecho primero en este parlamento y lo hemos hecho además también de forma directa en este ámbito con todos los sectores y asociaciones de cooperación hemos contado la situación tal como es ahora bien no me negará que hemos adquirido también compromisos

debatidos y adquiridos como compromisos para incrementar paulatinamente los fondos destinados a la cooperación a lo largo de la legislatura y hoy creo que estamos hablando de algo más que filipinas

la cooperación vasca para el desarrollo y todos los agentes que la conforman desde la visión descentralizada de su cometido y sin perjuicio de poder atender emergencias tiene vocación

en nuestro sistema de cooperación en el ámbito general de aplicación de los instrumentos

las que tienen acceso a nuestras ayudas en este caso a las de acción humanitaria

y reflexión sobre cuáles son esos mecanismos estructurales de reparación y eso señor unzalu

para finalizar le voy a pedir una mirada honesta a nuestro entorno en un año económicamente tan difícil como dos mil trece las instituciones vascas han destacado por mantener su compromiso con la cooperación al desarrollo sean en ayuda de emergencia

conoce usted de primera mano los datos reales de la cooperación en el estado usted sabe que los compromisos de ayuda adquiridos en dos mil trece en nuestra comunidad autónoma

con lo que ha ocurrido en otras comunidades de nuestro entorno sé que no es suficiente lo sé pero usted conoce el compromiso de este gobierno de cara a retomar a partir del próximo año dos mil catorce las iniciativas necesarias para devolver a esta acción política el alcance y la cobertura desarrolla

y entre estas acciones se encuentra lógicamente las que corresponden a las ayudas de acción humanitaria que es por lo que me pregunta en todas sus categorías y con una visión de medio y largo plazo y en todo caso desde la máxima coordinación posible con los gobiernos de los estados o de las naciones en las que se produzcan esas circunstancias dramáticas con las asociaciones que operan en la zona y con la coordinadora de ong de euskadi

muchas gracias presidenta señoras y señores parlamentarios señor lehendakari miembros del gobierno buenos días

pasado se aprobó una proposición de ley de iniciativa ante las cortes generales del estado sobre alteración de los límites provinciales consistente en la segregación de los municipios del condado de treviño y la puebla de arganzón

al territorio histórico de álava bien nosotros no lo consideramos desde mi grupo

el pleno del parlamento vasco aprobó el pasado día tres esa iniciativa señor lehendakari mi grupo

pero nosotros no consideramos la fórmula elegida hace unas semanas la mejor en clave de eficacia la mejor en clave de relaciones institucionales de conseguir el fin reclamado

tratando de residenciar la cuestión en las cortes generales que se modificara el estatuto

nosotros queremos conocer cómo valora el señor lehendakari el hecho de que a través de una iniciativa legislativa de una comunidad autónoma se trate de modificar el estatuto de autonomía de una comunidad autónoma vecina

la primera tiene que ver con el hecho de que dirija al gobierno una pregunta y pida por tanto cuentas y razones al ejecutivo en relación con una iniciativa que no es del gobierno

es cierto que el gobierno informó favorablemente la iniciativa pero la iniciativa como tal es de este parlamento la segunda cosa que llama la atención tiene que ver con el hecho de que tenga usted reparos en relación con una iniciativa que es pulcra y estrictamente constitucional y es que además no promueve ninguna reforma estatutaria de ningún tipo

estrictamente constitucional que se mueve desde el principio hasta el final en el marco de la carta magna fíjese quiere ampararse

pueden presentar proposiciones de ley en las cortes generales incluso proposiciones de ley orgánica y persigue además la alteración de los límites provinciales una competencia que con la ciento cuarenta y uno punto uno de la constitución es competencia clara

y por si esto no estuviera claro hay una jurisprudencia constitucional que lo ratifica en unos términos que son muy claros a este respecto hay una sentencia

parcialmente ratificada recientemente con ocasión de la sentencia sobre el estatuto que llega a decir que esta es una competencia nítidamente estatal

supra autonómico no es una cuestión autonómica independientemente de lo que opinen las comunidades autónomas al respecto dice el tribunal constitucional

supra autonómico y la competencia es del estado por tanto una iniciativa estrictamente constitucional no entiendo su reparo muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna

sí señor presidente señor erkoreka pues por eso le preguntaba yo al lehendakari

usted me contesta yo le acepto usted redactó seguramente el criterio del gobierno pero el lehendakari votó y aprobó el criterio del gobierno y votó la iniciativa o sea es una iniciativa suya es una iniciativa del gobierno es una iniciativa

es perfectamente normal que yo le pregunte por esa cuestión al lehendakari porque en esta cuestión

yo le decía al lehendakari no se lo tengo que preguntar a usted

por qué es decir en contestación reciente del lehendakari a la señora quiroga al señor maneiro en respuesta a preguntas en un pleno de control el lehendakari repetía varias veces bilateralidad

euskadi estado en lo relativo a diferentes cuestiones al concierto económico a su pretendido nuevo estatus a muchas cuestiones y al referirse a ello el lehendakari hablaba de una relación bilateral que requiere un respeto y requiere un reconocimiento mutuo

con la aprobación por su parte con el criterio favorable del gobierno y que igual redactó usted y su posterior votación en este pleno de la iniciativa legislativa ante las cortes generales para que treviño se desanexiones de castilla león y se integre en euskadi

rompen esa reclamación esa reivindicación de bilateralidad es decir por una ley del parlamento vasco se pretende reformar vía cortes generales

de castilla león es decir se acaba de dar un peligroso paso

en contradicción con lo que el lehendakari reclama a mí no me parece una buena fórmula de relación y sobre todo me parece un precedente peligroso que esperemos no estimule a otros parlamentos a otros gobiernos a propiciar iniciativas que busquen aspectos de nuestra legalidad estatutaria

a mí me parece que detrás de esta iniciativa aprobada por ustedes en esta cámara la iniciativa de reforma del estatuto de castilla león porque quiera que no eso va a suceder

de su señoría al lehendakari usted visitará el lunes la rioja y alcanzará acuerdos con los riojanos usted hace poco y esto está muy bien y le felicitamos por ello hace poco estuvo en navarra y también parece que las claves de colaboración se mueve todo eso pero

hace falta liderazgo y desde luego la vía escogida no es la adecuada muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

la iniciativa no es del gobierno efectivamente el gobierno

pero la iniciativa es de esta cámara legislativa no es del gobierno usted puede preguntar al gobierno lo que quiera

no es del gobierno es de esta cámara segundo lo de condicionar desde una comunidad autónoma el autogobierno de otra esto es lo que ocurrió lo que hizo castilla león en relación con el estatuto de gernika a propósito de treviño y lo ha hecho por dos veces

pretendió condicionar lo que ocurría aquí en relación

primero de la elaboración y después de la reforma del propio texto estatutario esto es lo que ocurrió y lo que hizo castilla león tercero no se preocupe por las iniciativas que puedan

la realmente importante está entroncada y bien entroncada en la constitución y último

que si esta iniciativa fracasa quede demasiado claramente de manifiesto que la culpa es de las mayorías absolutas del pp que del congreso y en el senado hay un pedido que

no se resuelve preguntando al gobierno se resuelve hablando con los diputados y senadores del pp

que ha impuesto la mayoría absoluta en el congreso de los diputados para poner de manifiesto que lo que los diputados y los parlamentarios del pp dicen aquí a propósito de que treviño araba da ellos no se lo creen

es clara es constitucional me sorprende que a usted no le gusta y depende de que prospere o no solamente de la mayoría que el pp tiene en este momento en cortes generales
convenza a sus compañeros por favor que si no van a quedar ustedes mal aquí eso es lo que le preocupa ya lo entiendo eskerrik asko erkoreka jauna

muchas gracias presidenta señor lehendakari

dado que está cerca la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se celebra el próximo veinticinco de noviembre

en la erradicación de este grave problema este llamamiento cada vez es más necesario la lucha contra la violencia de género está viviendo uno de sus peores momentos

la crisis nos afecta a todos y a todas pero aún más a los más débiles formando parte las mujeres maltratadas de los colectivos más vulnerables

los recursos necesarios para ello y el respaldo de las instituciones para poder salir de esa espiral de violencia es una violencia que no cesa

se han ido dando importantes pasos pero no suficientes señor lehendakari ya en mi intervención en esta cámara y ante una interpelación formulada por usted

y así como ya se puso de manifiesto tanto en mi intervención como en sus manifestaciones lehendakari la importancia que tiene la gestión pública y una respuesta unificada integral

nos parecen insuficientes por eso le pregunto si mantiene su criterio de dispersión de competencias en esta materia

además de responderle a su pregunta en este momento también tome la referencia de la pregunta por escrito presentada y permítame alguna precisión porque

gobierno vasco mediante decreto la comisión de seguimiento aprobó que emakunde siguiera el proceso pertinente permítame también otra precisión y es que la directora de emakunde compareció el día seis de mayo ante la comisión de derechos humanos e igualdad para presentar el proceso de reasignación de funciones y competencias en el seno del gobierno lo volvió a explicar el pasado día cinco de noviembre en este mismo parlamento y permita también una última precisión y es que esa reafirmación fue

del acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y de violencia sexual

también por unanimidad se ha calificado la situación actual como mejor que la precedente señora sánchez por lo tanto respondo el gobierno vasco ha utilizado

el criterio de la racionalización organizativa y el criterio de la mejora en la atención directa a las personas y creo sinceramente que la nueva organización del servicio resulta más eficaz desde el punto de vista de la organización interna del gobierno y más eficiente desde el punto de vista de la atención a las personas a quienes ofrece el servicio

señor lehendakari lo que está claro es que hasta su gobierno había una gestión unificada de todos esos servicios y ahora mismo todavía no sabemos cuándo se van a producir exactamente esos cambios a la consejería de empleo a la ertzaintza dónde tienen que ir las víctimas a qué ventanilla adecuada tienen que ir

dirección de atención esta será un retroceso porque esta dirección coordinaba hasta ahora todas las acciones el alarmante número de casos de

viviendo evidencia que el problema de la violencia de género es y debe ser considerado como de máxima importancia en las políticas de las instituciones públicas seguimos defendiendo

sea cual sea señor lehendakari a mi grupo parlamentario no nos parece serio

se nos diga en la comisión de hacienda que la reducción presupuestaria de emakunde es debida

y luego se nos conteste por escrito que no que todavía sigue integrada todo ese presupuesto dentro del presupuesto de emakunde y esas partidas

cuando se pasen las acciones por eso consideramos

en emakunde o fuera de emakunde porque los riesgos de perder todo lo conseguido hasta ahora en esta materia son muy altos y las reformas que se nos vienen encima impuestas a partir de primeros del dos mil catorce cuando entre en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local van a implicar nuevas acciones que tendrá que asumir su gobierno en materias de igualdad y en la lucha contra la violencia de género adelantémonos a esos cambios que vienen sino los que perderán serán las víctimas de violencia de género

es cierto que y le pido que crea que es así estamos hablando de un tema reflexionado analizado compartido y decidido decidido también que tendrá el próximo martes en consejo de gobierno con una modificación del decreto de áreas donde también esto se concrete es una reflexión a la que hemos procedido durante muchos meses

en todo lo que ha sido la respuesta en la primera intervención de lo que ha sido también la aprobación o el criterio de unanimidad en la comisión interinstitucional un cambio a mejor modélico por su transparencia participación y consenso tanto institucional como profesional es un tema

y es al que usted ha hecho referencia también en su primera intervención y es que en estos últimos diez meses he respondido personalmente a catorce preguntas parlamentarias sobre esta cuestión

y criterio compartido de manera unánime y he intervenido ofreciendo toda la información requerida

a las mujeres víctimas de maltrato y de violencia hemos contado para ello con la opinión experta y el consenso de las personas profesionales implicadas directamente en esta atención

buscamos lograr una mejora sustancial de la atención directa a las personas a las que se está ofreciendo este servicio manteniendo en todo caso el servicio de atención veinticuatro horas a la víctima

en el consejo de dirección de emakunde en las reuniones en las que yo he participado esto es lo importante señora sánchez ofrecer

que lo necesitan y ese es nuestro compromiso eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el grupo vasco y popular sobre materia de foralidad en la adminstración local

por lo menos señor maeztu agradezco en todo caso lo que dice parte de su enmienda

literalmente con el entramado institucional cambian los servicios que recibiremos de las instituciones atacando el nivel de bienestar que hemos alcanzado y que tanto ha costado lograr

el esfuerzo realizado por las instituciones de este país para alcanzar el grado actual de bienestar algo hemos avanzado algo

preservando la singularidad del sistema institucional y financiero derivado de nuestros derechos históricos y gracias a las enmiendas presentadas por el partido nacionalista vasco se garantiza el respeto a la singularidad de euskadi y por lo tanto la aplicación en nuestro territorio se ajustará a esa singularidad gracias a las enmiendas del partido nacionalistas vasco eskerrik asko